ondorioak pairatu dituztelako a muchos y muchas parlamentarias les sonará ese famoso artículo ciento sesenta y nueve del convenio de la oit en cuanto al derecho de

muchos más años que yo en este parlamento y de cuántos países han venido a decirnos lo mismo

hablando de estas puedan resultar menores como ataques al derecho

básicos mediante cosas tan fáciles que también pasan aquí y también las denunciamos como la manipulación de precios los cortes arbitrarios como es el caso por ejemplo de guatemala con unión fenosa claro que todas las empresas no hacen estas cosas

pero tampoco son gotas en un océano es la propia dinámica del capital la que está produciendo cada vez más espacios de impunidad

donde ese capital actúa de una forma voraz con las personas y la naturaleza

ni más ni menos es regulación y hacer desde donde podemos que es aquí y ahora nada más y nada menos regulación y coherencia en la euskadi del bien

en el marco de referencia para la coherencia de políticas para el desarrollo en el país vasco eta baita ere diru publikoaz finantzatutako analisi honetan euskadiko

no de ley coherencia porque lo hemos visto en la negociación unas áreas del gobierno van por un carril

quizás van en dirección contraria y así no se puede estábamos dispuestos y dispuestas a ir más despacio renunciábamos en un primer momento a la capacidad sancionadora de la que hablábamos y que todo el mundo nos decía con un tono a veces paternal no no eso no se puede eso no se puede hacer renunciábamos a eso

la joya de la corona de esta iniciativa a cambio de comprar un marco que suena bien lo tengo que reconocer pero del que no conocemos el detalle no conocemos

el marco del futuro plan vasco de empresas y derechos humanos que ya estaba aprobado hacerlo la planificación de la agencia vasca de cooperación comprábamos entrar ahí caminar más despacio merecía la pena el esfuerzo pero claro

quiero entender que lo que decía antes de las presiones de distintas áreas del gobierno quiero entender aunque no esté ahora aquí las presiones del departamento de la señora tapia

en otras áreas lo que pedíamos lo vuelvo a decir era coherencia tenía tres puntos y tiene tres puntos esta proposición de ley hablo en pasado porque por lo que nos han trasladado anteriormente los y las portavoces pues no va a ser aprobada o igual tenemos

era revisar y condicionar las relaciones que tenemos con países vulneradores de derechos humanos evidentemente de mi grupo

soy y somos partidarios del boicot total al estado genocida de israel por ejemplo solo estamos diciendo revisar y condicionar esas relaciones fomentar las buenas prácticas de internalización basada

se cambie y se fomenten las buenas prácticas lo vuelvo a decir con una base

la agenda dos mil treinta e incluso la adaptación de la agenda dos mil treinta de euskadi con la que saben que somos especialmente críticos como dejamos claro en esta tribuna y también el documento de internalización de la propia coordinadora de ong y bueno pues a las tres se les ha dicho

los que sabemos lo que hay por detrás pues sabemos que es totalmente insuficiente

la mamia de la iniciativa ese espacio de

el nombre nos daba igual era un espacio plural no venían aquí

era una propuesta es una propuesta porque la seguiremos haciendo que septiembre está aquí a la vuelta de la esquina

donde iban a estar empresas gobiernos sindicatos ong cooperativas el ararteko etcétera

para hacer formación sensibilización y diálogo entre todos esos actores para que nuestras prácticas fuera sean lo más coherente con los documentos que tenemos aprobados aquí y que sean coherentes también con la práctica que las empresas tienen que realizar aquí en todas esas materias

habíamos propuesto para que hablase sobre política pública

las denuncias que podían recibir en ese centro directamente vinculadas a la acción exterior de las empresas y que elaborase propuestas para cambiar

o el plan de acción exterior eso es lo que decíamos y por último que eso es a lo que renunciábamos en el caso de que hubiera habido un acuerdo era el tema de las

por ahora porque no vale tener una relativamente buena política de cooperación internacional y un

por otro lado o en dirección contraria no vale tener un buenísimo documento de coherencias de políticas

y es anterior incluso pero que se quede en lehendakaritza no nos vale coherencias todo

sentido no vale tener aprobada esta ley una ley que se

de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción comercialización y financiación de armas y el veintisiete de marzo del dos mil diecinueve la señora tapia me contestó que las empresas

subvenciones públicas del gobierno vasco y sapa en dos mil diecisiete no pero en años anteriores sí

y voy terminando este modelo de internacionalización tiene los días contados va a pasar lo mismo que con los negacionistas del cambio climático por eso es importante la coherencia desde un país además tan pequeño como el nuestro

una herramienta mediante la cual los gobiernos en este caso el gobierno vasco pues pretende salir de las recesiones que tenemos en el sistema y poner casi todos los huevos en la cesta de la exportación pues tiene sus riesgos también macroeconómicos unimos la capacidad de las empresas que tienen sede aquí

en este mundo desregularizado unimos con que esas empresas puedan competir en unos nichos de mercado que son cada vez menores que cada vez son más pequeños y son por tanto menguantes y están luchando nuestras empresas en un marco de rentabilidad y de competitividad que lo que hace siempre

esa lógica lo que hace es que los derechos humanos laborales y medioambientales siempre se queden en un segundo lado teníamos oportunidad por tanto de un gran

para esos grandes acuerdos de país que también hacen falta

con el trabajo no remunerado de las mujeres y sostenida también por esos países del sur que están intentando hacernos llegar esas pocas

trasnazionalek besteak beste eta adierazi behar dugu que estas empresas transnacionales desarrollan una estructura de gobernanza global en favor de esos valores hegemónicos en las que participan organismos multilaterales

públicas regionales estatales y locales y también actores ilícitos giza eskubideen defendatzaileen erailketa

eta horien bi herenak lurraren defendatzaileak dira son defensoras ambientalistas es el precio

asesinados pertenecen a movimientos medioambientales

se han reportado más de ochocientos asesinatos y esto mirando los datos a mediados del dos mil dieciocho estando ya a mediados de dos mil diecinueve

sobre la represión y la coacción que se da en algunos países latinoamericanos demuestra que aun hoy por actualizarse es una práctica represiva de un continente el continente latinoamericano que atrae la atención de poderes económicos y empresariales debido a los recursos naturales que posee

los poderes estatales hacen caso omiso a los derechos de los pobladores indígenas entre otros de algunas zonas de honduras que bien conocemos la situación de méjico de colombia que también conocemos bien la situación

y las mujeres ellas son las principales defensoras de la vida y ayer también lo decía amaia pérez orozco

de lo cotidiano del buen vivir son las que están poniendo sus cuerpos para defender la vida y por ello son víctimas de violaciones de abusos sexuales de hostigamientos a sus familias se ven expuestas a campañas de desprestigio que cuestionan por ejemplo sus compromisos familiares y aquí

pasa por impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre las empresas trasnacionales

que obligue a las empresas a establecer análisis de riesgos en sus cadenas de suministros no hay un marco jurídico

por lo que pueden hacer en el extranjero cosas que no harían

dogmas o frente a inercias o simplificaciones

un ejercicio constante de poner en duda aquello que estamos haciendo una reflexión crítica del camino que estamos tomando y una propuesta de diagnósticos propuestas y agendas compartidas referencias a las que dirigir nuestros esfuerzos y nos toca en estos momentos ser imaginativos

al que vamos a transitar que no conocemos pero seamos imaginativos y hagámoslo conjuntamente como dice gonzalo fernández en alternativas al poder corporativo

agendas que se posicionen explícitamente en defensa de la vida asumiendo así su carácter vulnerable diverso eco e interdependiente que tiendan hacia lógicas de integralidad y globalidad aunando relatos dimensiones y ámbitos de actuación en una lógica de articulación global que se definan desde el concepto de transición combinando la respuesta ante las necesidades inmediatas y urgentes con la determinación por avanzar que pretendan incluir e interseccionar agendas y sujetos diversos desde la corresponsabilidad cuando sea posible y que finalmente desarrollen la audacia para navegar la complejidad y la incertidumbre

capitalista desde parámetros emancipadores porque eso es lo que buscamos agendas emancipadoras para todas las ciudadanas

que la defensa de los derechos humanos económicos sociales medioambientales debe ser integral en euskadi y fuera de euskadi observando siempre y trabajando siempre porque se cumplan esos objetivos

y también en las subvenciones y ayudas públicas a las empresas una tarea que sin ningún lugar a dudas debe ser colectiva con implicación de la sociedad

públicas de los avances de los impactos de los incumplimientos de las soluciones de las medidas sancionadoras y todo ello siguiendo

proteger respetar y remediar en este compromiso político la formación la sensibilización el asesoramiento

deben ser igualmente protagonistas a todos los demás agentes de participación que antes había mencionado en este compromiso han de trabajar todos los gobiernos

con especial atención a las empresas transnacionales

y también hace más difícil el control de las conductas empresariales y de determinadas conductas económicas y sociales estamos obligados a defender o a atender ante esta realidad a actuar

que sobre la globalización puedan darse y a defender una competencia social y leal basada en valores universales y por lo tanto en ese compromiso estamos siempre los socialistas lo que pasa en nuestro país lo que pasa euskadi

lo que pasa fuera de nuestro país es de nuestra incumbencia y por ello también somos corresponsables en el mundo que vivimos la violación de los derechos humanos y las agresiones y daños medioambientales son más frecuentes y extensas de lo que conocemos o imaginamos

enfrentarse a esta realidad implica también un trabajo activo de la unión europea y todas

la generación de empleo y riqueza se produzca donde se produzca debe estar acompañada de empleo de calidad y de una riqueza generadora de igualdad

el alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos ya cuenta con principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos como he mencionado anteriormente

encuentran vacíos importantes para acceder a la justicia cuando hay violación de derechos humanos y por lo tanto hay que avanzar

necesitamos instrumentos internacionales para enfrentarnos a esta realidad y entre ellos un instrumento jurídico vinculante del que se viene hablando y reclamando

necesitamos protocolos para compartir actuaciones entre las autoridades diplomáticas y los defensores de los derechos humanos y medioambientales en los estados

empresas españolas hay que dar cobertura económica para programas de protección

hay que fomentar la adhesión voluntaria de empresas multinacionales para garantizar

de respeto a los derechos humanos hay que hacer muchas cosas para que el desarrollo económico el empleo la competitividad

defiendan la eficiencia social y ecológica hay que evitar la reducción de derechos la precariedad la inseguridad de las personas o la destrucción de recursos naturales sabiendo que estos problemas tiene dimensión mundial

en este nivel desde todas las instituciones se puede aportar se puede aportar desde este parlamento desde el gobierno vasco desde el gobierno de españa desde la unión europea desde los organismos internacionales y refiriéndome parlamento y a este gobierno efectivamente desde aquí también se puede aportar se puede aportar en el diálogo y los acuerdos con el sector privado en estas direcciones se puede aportar completando el marco estratégico que ya tiene establecido

se puede aportar con espacios de encuentro y diálogo de diferentes actores institucionales y sociales se puede aportar con acciones y herramientas de sensibilización

y se puede aportar con medidas de seguimiento de asesoramiento y de rendición de cuentas en estos términos en este compromiso político es donde nos hemos posicionado

es el ofrecimiento que hacemos al conjunto de los grupos de esta cámara y esperamos y deseamos que pueda contar con el apoyo de todos muchas gracias eskerrik asko

euskal enpresak kanpoan el derecho internacional

muy labur labur hay un primer código de conducta un primer intento de código de conducta fallido es cierto en el año mil novecientos setenta y cinco que fue más tarde sustituido por

plan de naciones unidas que fue presentado por el secretario general entonces kofi annan en mil novecientos noventa y nueve en el foro económico mundial de davos en el contexto

a estas alturas en los objetivos de desarrollo sostenible como decía

diez principios universalmente aceptados para promover el desarrollo sostenible

en las actividades y la estrategia de negocio en las empresas hay

y es la mayor iniciativa de responsabilidad social empresarial del mundo respaldado por ceos de las empresas que lo componen

ofreciendo a sus signatarios una amplia gama de recursos y herramientas de gestión para ayudarles a implementar modelos de negocio y desarrollo sostenible decir que este global compact este pacto mundial de naciones unidas también está presente en euskadi y en él participan más de

y también el grupo spri ha organizado ya jornadas divulgativas al respecto con nuestro entramado empresarial siguiendo adelante con el marco internacional

prieto también se adoptaron unos principios rectores en naciones unidas sobre empresas y derechos humanos y se creó un foro en este sentido que se reúne anualmente en ginebra y a partir del cual se observa el movimiento

tanto regionales como nacionales podemos ver ya planes de empresa y de derechos humanos en gran bretaña suecia dinamarca

en chile o en indonesia también se produjo un comentario general en dos mil diecisiete un comentario general del comité

derechos económicos sociales y culturales de naciones unidas hablando de las obligaciones de los estados en virtud del pacto internacional

en el contexto de sus actividades empresariales por tanto tenemos ya suficientes instrumentos

internacional las empresas están cambiando están girando

desde la responsabilidad social corporativa a la responsabilidad corporativa en materia de derechos humanos ya están dando cuenta los estados de sus obligaciones internacionales teniendo en cuenta

las actuaciones de sus empresas en terceros países

del respeto a los derechos humanos de sus empresas en esos terceros países en segundo lugar el segundo bloque del que quería hablar

en esta tribuna me ha tocado defender en otras ocasiones cuestiones referidas a marcos globales como cambio climático etcétera

muy rápido pero poner de manifiesto el marco estratégico de coherencia de políticas que ya se ha hablado dos mil dieciséis

en torno al desarrollo humano sostenible todo el plan de gobierno de la legislatura de la undécima legislatura alineado en ese desarrollo humano sostenible

que ya incorpora los con un enfoque de derechos humanos y que además está perfectamente incardinado

que prevé además un sistema de seguimiento y evaluación de la actividad desplegada en su marco

por la parte de las áreas de derechos humanos y de cooperación en dos mil dieciocho ha aprobado el cuarto plan director de cooperación para el desarrollo dos mil dieciocho dos mil veintiuno

giza eskubideen alde y una de ellas es empresa y derechos humanos con el objetivo claro de alinear el marco normativo programático y operativo a los avances internacionales que he comentado antes y con una línea de actuación clara que es elaborar un plan de acción de actuación en empresa y derechos humanos y ponerlo en marcha nuestra enmienda

este plan director de cooperación marca esta línea de actuación pero no le pone fecha y en nuestra enmienda se retoma esta actuación

una serie de objetivos muy claros ayer mismo la agencia de internacionalización firmó el acuerdo

un acuerdo con cofides hoy está

un acuerdo con cofides para impulsar la financiación de proyectos con impacto social y medioambiental en el exterior teniendo en cuenta el desarrollo sostenible los objetivos de desarrollo sostenible cien millónes de euros para este fondo para estos trabajos de impulso de la mano de cofides que es la única entidad financiera que está definida por la propia naciones unidas como una entidad innovadora acreditada para poder trabajar

unión europea por tanto vemos que también el gobierno vasco está

con todas estas cuestiones en la comparecencia que en diciembre

de acción exterior de este parlamento ya se extendió en una serie de cuestiones y no las voy a repetir pero sí marcar que lo que en aquel momento en diciembre el consejero nos decía que se iba hacer o que estaban pensando en hacer se ha hecho nos hablaba de que se iban a poner

este tipo de cuestión ya están en las convocatorias de dos mil diecinueve ya están contempladas y también está en marcha la plataforma basque country de apoyo a la licitación a las empresas vascas

nuestras empresas en nuestras empresas lo decía también en aquella comparecencia

son reconocidas por su seriedad por su profesionalidad y por su calidad de trabajo

y con su trabajo son unos de los mejores embajadores con los que euskadi cuenta

esto es así no tenemos constancia de desmanes no tenemos

en estas cuestiones las empresas vascas van a otros países e intentan trasladar su modelo

trasladan los patrones de cumplimiento laboral ambiental y de todo orden de uso común en euskadi nuestras empresas también por su tipología y por sus características no van buscando precios baratos van buscando abrir mercados

son parámetros diferentes a los que se pueden mover empresas como por ejemplo

estas empresas van buscando esa apertura de mercado y podemos decir que cumplen escrupulosamente

lehendakari consejera señorías buenas tardes bueno ya de este asunto ya hemos hablado la verdad que lo hemos hecho de una manera reiterada también en comisiones lo hemos hablado en la comisión de

también se ha tocado en los debates que hemos tenido con otros documentos del gobierno y

iniciativa o que el asunto o que el tema que se nos presenta tiene interés cada día está más presente la exigencia a los actores

industriales que operan en la economía y en la generación de empleo de que las prácticas sean cada vez pues mejores más acordes en general con el respeto de los derechos laborales con la no explotación con el salario digno con las condiciones de trabajo correctas eso lo hablamos en términos

intentando que se garantice en el marco de la actividad en el exterior de las empresas de nuestras empresas o de las empresas vascas en este caso y también

que esas medidas o que esa situación va mejorando o por lo menos las medidas de control y de análisis

se opera fuera en el exterior por parte de las empresas pues cada día es más fácil de identificar y de conocer y de que esas ineficiencias también o esas dificultades o incluso actitudes poco éticas

porque cada día hay más control bueno yo no voy a repetir ya se ha hablado de los programas a nivel internacional que existen auspiciados por naciones unidas o por otros organismos los

establecidos en sus ámbitos de cooperación al desarrollo y de relaciones exteriores también el hecho de que las empresas

de los países de los estados o de los territorios y que en ese sentido

se está avanzando más por eso yo creo también que esta iniciativa

interesante en el fondo pero se mueve en una especie de desconfianza estructural en las empresas

general más de incumplimiento y más de posibilidad de conculcación de los derechos humanos

más en la confianza en las buenas prácticas o en los acomodos a la coherencia y eso no es así desde luego yo creo que fundamentalmente ninguna duda de que por parte de las empresas vascas hay mucho más acomodo a la coherencia y buenas prácticas y una actitud responsable bien empresarial

más que la desconfianza de entender que pueden ocultar

poco éticas o inmorales en ese sentido está claro que por eso mismo pensábamos que en el fondo de la iniciativa que podía tener un fondo

tanto proponentes como enmendantes iban a alcanzar un acuerdo en este tema pero

más ajustada a la realidad o a las necesidades la enmienda de la totalidad de los grupos que apoyan al gobierno y yo creo que antes de abordar

antes de abordar un planteamiento maximalista como el que nos ofrece la proposición no de ley

con una creación de estructuras administrativas alrededor de todo esto con una implantación bueno luego parecía que se podía retirar pero

es muy difícil crear una estructura administrativa para un control de esas características hay que confiarlo a otras posibilidades yo creo en este momento y sobre todo es que no es realista luego

la situación antes que todas esas cuestiones tan maximalistas yo creo que bien podríamos encargar y yo creo que eso es lo que se va a hacer que sepamos y encargar al gobierno vasco

de actuación en relación con las empresas en el exterior y en relación con la exigencia de cómo hay que cumplir parámetros internacionales no solamente estamos hablando

de los propios ustedes también han podido hablar de los objetivos sostenibles del milenio en el tema de cómo el objetivo número ocho es muy claro en cómo crear empleo

en ese sentido la elaboración de ese plan nos va a permitir varias cosas primero conocer la situación y hacer un análisis de la realidad

claves para dar pasos en caso de que la actividad de las empresas en el exterior no se mueva en parámetros

nosotros entendemos que sí se mueven en parámetros la actividad de las empresas vascas en el exterior razonables y de respeto en relación con lo que estamos hablando y eso nosotros también vimos con interés porque también le preguntamos incluso al lehendakari en su día

del gobierno en relación con lo que se nos había expuesto por parte de la coordinadora de

los estudios que habían hecho la coordinadora de ong de euskadi sobre análisis de la política

empresarial del gobierno vasco de dos mil catorce dos mil dieciséis pues solicitamos la presencia del gobierno en la comisión de acción exterior lógicamente

que se planteaban en ese informe pues queríamos saber cómo las abordaba qué análisis hacía

detalles de lo que es el plan del gobierno de internacionalización ya se han referido a él no me voy a referir yo del dos mil diecisiete dos mil veinte

a entender que en ese marco y en ese plan y sabiendo que se es conocedor

sobre lo que se puede analizar y avanzar mucho más pero bueno ya se avanza y se manejan conceptos a la hora de vincular las empresas pues se habla de

y hay que saber y hay que formar a las empresas seguramente y hay que tener diálogo con las mismas y tiene que haber entendimiento entre las empresas los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos que desde luego cumplen un cometido esencial porque

documento de la coordinadora de ong nos sirve a todos le sirve al gobierno nos sirve a todos

están observadas que los temas como todo hay que

economía de la paz criterios puestos en práctica

hay que darles de contenido pero efectivamente son responsabilidad social con contenido o pasos

cómo los materializa en relación con lo que le vamos a pedir hoy mi grupo el grupo popular confía en el buen hacer de las empresas vascas en el exterior confiamos plenamente

siempre ha estado ligada a posturas interesantes de desarrollo personal también cercanas al trabajador

no nos cabe ninguna duda de que esa actitud de las empresas vascas tendrá también continuidad en las relaciones empresa trabajador en otras partes del mundo

entendemos que eso es interesante y vamos a apostar por esto sin perjuicio

hay riesgos y de que hay situaciones desde luego

muchas veces las empresas son las mejores embajadoras de un país y son las que dan la imagen de ese país y nosotros queremos tener una buena imagen por ahí así que nuestras empresas

un sistema de sanciones a empresas vascas en su actividad en el exterior vamos a ver

crear un sistema de seguimiento exhaustivo con las condiciones administrativas o

un gobierno autonómico es imposible hacer un seguimiento de toda esa actividad

por todo el mundo o sea que si no se puede hacer un seguimiento con garantías es muy difícil sancionar porque

y segundo porque creo que no es necesario creo que no es necesario en relación con ese procedimiento exhaustivo

de desconfianza que yo creo que tiene que ser neutralizado en relación con la actividad de las empresas

dijo en la comparecencia en comisión de asuntos europeos y acción exterior y lo dijo o sea si lo dice

que no le consta al gobierno lo dijo no le consta al gobierno vulneraciones de derechos humanos por parte de empresas vascas pues también tenemos que entender que eso es un buen dato igual no lo conoce al cien por ciento vamos a suponer que es muy difícil controlarlo todo pero en cualquier caso eso también da datos

entender que tenemos que aplicar instrumentos adecuados proporcionales y no maximalistas

en el conocimiento de las alteraciones de las vulneraciones de derechos humanos o de actitudes

al que podemos acudir todos y cada uno y el que lo identifica desde luego de una manera clara en relación con neutralizar malas prácticas o

allende las fronteras o sea que siempre estarán los tribunales de justicia si se observan esas malas prácticas en derechos humanos o en comisión de delitos efectivamente nuestro diagnóstico es un tema importante efectivamente yo le aconsejo al señor martínez a la señora etxebarrieta traer

la cuestión al parlamento lo hemos hablado nos ha preocupado también alguna de las consideraciones que se nos han hecho por las organizaciones no gubernamentales pero yo creo que tenemos los instrumentos suficientes con lo que hoy vamos a probar en relación con mi grupo va a probar

a votar con sus palabras y no con su voto la iniciativa original porque veo en la literalidad de sus palabras o en la inmensa mayoría de ellas que estaba de acuerdo con la iniciativa

lo hemos hablado estos días en ningún momento y si es así rectifico

desde antes de entrar a este parlamento ya solo con el documento de coherencias es un paso importante lo que pasa es que luego hay que llevarlo a cabo

y el debate principal aquí es el de la voluntariedad nosotros incluso una de las cosas más

utilizar ese lenguaje era el tema de las sanciones estábamos apostando justo por la voluntariedad que se premiase a quien lo hiciera bien es decir que en las clausulas sociales o sea en las cláusulas de licitación se estableciesen cláusulas

más puntuación que es en el marco competencial en el que nos estamos

si comparamos las iniciativas de dónde podíamos haber llegado y de donde

un discurso genérico pero importante de revisión de que bueno pues una pensada a las relaciones comerciales y exteriores que tiene el gobierno

una referencia la segunda es esta misma de las subvenciones y no está

claro al pedir que votemos eso se nos está pidiendo un voto de confianza a un plan que nosotros no conocemos porque si tenemos que depender

que es el responsable de esa subvención que usted ha citado tiene una sensibilidad especial si el siguiente viceconsejero tiene la sensibilidad de un ficus pues esa

y eso qué quiere decir que ese plan vasco de empresas y derechos humanos que nosotros habíamos comprado el marco que ya sabemos

los acuerdos habíamos comprado el marco desde los dos grupos de izquierdas de la oposición lo que queríamos poner nuestra impronta entonces no vamos a dar aval a una cosa que no primero que ni conocemos más allá de que la música suene bien y

de la federación de cooperativas a israel hemos recibido la información de que se va a volver

en el que se habla no ya de que se vaya a israel a conocer las pequeñas

del buen hacer de israel en la recuperación del hebreo en el mantenimiento de unas relaciones correctas con la población y el entorno una referencia también al desarrollo de los derechos de la mujer en un contexto que hablan que israel se desenvuelve si no me equivoco en un contexto

dictaduras no sé creo que estado más genocida que el de israel habrá

en ese viaje como ejemplo a israel la verdad que creo que por ejemplo

que es colombia que es el grupo mondragón y el trabajo que está realizando con el proceso

investiguen las empresas vascas que estaban y que están metidas en ese proyecto

colombia por tanto por eso estamos hablando de que los pasos son totalmente insuficientes

una virtualidad muy grande que este parlamento en ese caso con esa transacción que hubiera hecho el grupo popular pero bueno pongámonos que la inmensa mayoría de este parlamento hubiera aprobado la transacción que estábamos trabajando qué gran lección estaríamos dando para las siguientes legislaturas que seguramente algunos y algunas de nosotros no estemos aquí pero esa política quedaría aprobada y con hacia el exterior con una imagen esta vez sí de país y es la segunda vez que

como paso también con el documento de visión europea que somos la oposición los que tenemos que traer los debates al parlamento aun sabiendo

una oportunidad de perderlos pero creemos que esta es la cámara donde se tiene dirigirse cuando hablamos de un plan vasco de empresas y derechos humanos fíjense la diferencia entre un plan del gobierno vasco a un plan vasco o una visión de euskadi sobre europa o una visión

tener visiones como país hagámoslas entre todos y bueno como vamos a volver a traer iniciativas similares después del verano pues volveremos a hablar de ello y al compañero barrio

acercamiento en alguna de las posturas en los discursos generales pero también cuando hablamos de las empresas vascas que hay evidentemente empresas que hacen bien las cosas pero estamos también en el territorio del estado con más conflictividad laboral o sea que

poco en contexto lo del buen hacer de las empresas vascas eskerrik asko

el pie esaten den moduan para hablar sobre la responsabilidad social corporativa y también

expertos y expertas denominan que se ha puesto en marcha esto la responsabilidad social corporativa o el propio global compact para que las

lo han puesto en marcha con el objetivo de legitimar sus propias operaciones restaurar su imagen de marca desactivar las críticas producidas por los efectos de sus actividades evitar la asunción de normas vinculantes e instalar un nuevo modelo de relaciones

unilateralidad no exigibilidad y autorregulación por encima de otras consideraciones y justamente lo que hoy traíamos era lo contrario era que no fuese voluntario que fuese en común que se debatiese y que hubiera espacio amplios justamente entre empresas

a este debate mientras no lleguemos a vernos las caras no va haber ningún tipo de cambio posible y solo quería acabar con un caso con el caso

no sé si lo conocéis se encuentra en el golfo de méxico en el océano pacífico está

en el suroeste de méxico es una región de doscientos veinte kilómetros de longitud

cinco pueblos indígenas habitan esas tierras y dada las condiciones de sus vientos y sus características topográficas constituyen una de las zonas de mayor potencial de generación de energía eólica a nivel mundial no en vano

ahí se construye el corredor eólico más grande de américa latina en este corredor eólico

gas natural fenosa acciona y renovalia y bueno la verdad que

el documento en el que se habla de este caso que ha hecho ecologistas en acción

el fondo de mujeres donde también hacen un análisis de género del impacto que tiene

del trabajo que está haciendo iberdrola desde dos mil ocho aquí

ha inaugurado dos plantas en la ventosa con el nombre de parques eólicos méxico

y bueno me voy a pasar directamente a la conflictividad social y la vulneración de derechos humanos que se da

todas las comunidades han venido denunciando la sistemática vulneración de derechos por parte de las transnacionales eólicas

lo primero que pusieron de manifiesto fue la falta de información y transparencia

forzar la firma de contratos para la población local la ausencia de consulta previa e informada se añaden engaños

abusivos incumplimiento de los pagos acordados así como la falta de información sobre los impactos socio ecológicos reales en este caso estrategias de injerencia división y destrucción del tejido social

se ha acusado a la compañía de haber corrompido tanto a funcionarios municipales como a algunos líderes campesinos que habrían sido sobornados para que actúen a favor de la empresa las comunidades han denunciado la invasión y expropiación de los terrenos y adicionalmente las organizaciones sociales han acusado

de hacer uso de la fuerza policial en contra de las movilizaciones y no me da tiempo a leer todo pero quería acabar con el hecho más grave que fue

en dos mil trece de un integrante de appg

pese a que la compañía se desvinculó de los hechos mediante un comunicado de prensa

originada por sus actividades seamos valientes y adelantémonos a que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta

lo principal del debate es la voluntariedad y yo diría que no es la voluntariedad que es la eficacia porque precisamente es ahí donde está

estamos muy cercanos porque no podemos definir las cosas que son de una manera de forma diferente a cómo son por lo tanto cuál es el valor de los derechos humanos cómo se deben de aplicar cómo se deben de defender una economía que respete

que se proteja y se respete el medio ambiente que se haga una competencia leal que la competitividad económica tenga también contraprestaciones sociales que la riqueza no sea solo un exponente de la modernidad sino que también sea el reparto

de forma diferente pero cuando usted viene aquí a esta cámara junto con eh bildu a traer una propuesta para que

y para que se la encargue al gobierno usted tiene que medir cuál es la dimensión de lo que está proponiendo y es en la dimensión de lo que está proponiendo donde está la diferencia y por eso nosotros tenemos una posición política diferente

que además es de reciente aprobación que ha tenido un trabajo muy intenso en el congreso de los diputados porque se ha insistido mucho sobre ello y en él se plantean aspectos de carácter de intervención ante este problema de carácter judicial de carácter extrajudicial de carácter legislativo bueno otro tipo de mecanismos para hacer reclamaciones y usted sabe que siempre los debates confluyen

el marco de un país porque hay que seguir la actividad de las empresas trasnacionales más allá de euskadi más allá de españa más allá incluso

porque se expande por el conjunto de los continentes y para poder actuar en ese tipo de situaciones hay una reclamación que es unánime en la mayoría de los países incluso de los que están más avanzados a este respecto entre ellos francia donde tienen un desarrollo importante

es decir de una acción concertada a nivel internacional y sabe que en eso es fundamental esa cooperación y esos vínculos internacionales y claro si usted habla de que el gobierno vasco tenga instrumentos para

de todas las acciones empresariales de todas las empresas que exportan

si usted plantea que el gobierno vasco sancione si usted le pone deberes que

incluso con la capacidad de operar en otros estados en otros continentes claro la situación es prácticamente imposible

tiene que tener dimensión y usted plantea una dimensión que es muy difícil de abordarla desde aquí por eso en los conceptos estamos de acuerdo

digamos que una cierta sintonía por no decir unanimidad para defender esa protección de los derechos humanos y para que las prácticas de nuestras empresas estén acordes a esos y para que esa actividad económica empresarial sea una actividad razonable para las personas

y que todo el mundo tenga acceso a unos mínimos a un empleo digno y a unas condiciones

estamos de acuerdo claro usted luego no puede mandarle al gobierno vasco a que resuelva el mundo mundial igual

me parece que la tarea es un poquito grande y por eso lo que hemos hecho enmienda que hemos presentado el grupo nacionalista y nosotros ha sido dimensionar a lo que se puede hacer desde aquí todo ese conjunto de conceptos

yo creo que esto no es motivo ni para la tristeza ni para la decepción ni para

sigue que es el objetivo o los objetivos políticos y lo que pasa que hay que adecuar los instrumentos a la realidad política de lo que puede hacer un gobierno

tenemos que aceptar o tenemos que confiar bueno ahí está puesto es un plan con una serie de cuestiones que tiene que atender y tiene un plazo de un año y eso nos marcaría

de planificación clara concreta encima de la mesa que en ese marco de un año nos va a poner el arranque de la siguiente legislatura pues perfectamente articulado

es mejor avanzar poco a poco pero con fuerza generando consensos y no avanzar con avances

pero que generan ruptura y desafección eso puede ocurrir

la posibilidad de hacer un tratado internacional en esta materia jurídicamente vinculante

la diferencia es que los principios rectores están ratificados por el consejo de derechos humanos y están ampliamente aceptados por los países miembros y sin embargo

para un tratado internacional jurídicamente vinculante pues ya no genera tantas adhesiones y por tanto lo hace más débil

desde nuestras competencias y desde nuestras responsabilidades tenemos que ir trabajando paso a paso para ir consolidando una forma de hacer que yo creo

que nos vamos a ir poniendo de acuerdo en la letra en la medida en la que vayamos viendo

trabajos en equipo para ir desarrollando ese plan de derechos humanos estoy segura de que nos vamos a ir encontrando y siempre pongo

de cómo se ha trabajado durante dos décadas en medio ambiente generando esos consensos

acuerdos voluntarios con las empresas las empresas vascas han hecho un trabajo realmente ejemplar en ese camino estoy hablando desde finales de los años noventa hasta ahora y

han demostrado que no es contradictoria la competitividad de las empresas el respeto al medio ambiente en ese caso y ahora también van a demostrar que no es incompatible con el respeto a los derechos humanos y al progreso humano por tanto yo animo a todos a votar nuestra enmienda o por lo menos a no votarla en contra porque no creo

que nadie pueda decir que no a lo que está encima de la mesa invito a vencer esas desconfianzas creo que

buenas tardes gracias señora presidenta señora consejera señorías

el tema que hoy nos ocupa tampoco es nuevo para esta cámara ya en dos mil diecisiete hablamos

y fuimos testigos del desacuerdo que existía entre el gobierno vasco e itelazpi sociedad anónima sociedad pública operadora de telecomunicaciones

para la ubicación de sus centros de telecomunicaciones monte publico gestionado por las juntas administrativas con la supervisión y asesoramiento de la diputación foral de álava la gestión de los recursos de los montes

el resto se deriva de ayudas de financiación por parte de la diputación y en algunos casos también por parte de los ayuntamientos correspondientes participan en la gestión de todo aquello que se refiera al monte hablamos de pastos hablamos de leña también sistemas

también en aquellos sitios donde se han instalado parques eólicos participan

ocupación de sus montes cuando han

y llegar a acuerdos para la contraprestación correspondiente para el uso del monte para la instalación de estos centros la respuesta era

argumentando que son una sociedad pública un servicio público y sistemáticamente recurrían cualquier intento de regularizar esta situación llegando a recurrir las ordenes que la diputación foral de álava dictaba para regular la ocupación de monte público por itelazpi para la instalación de los centros de telecomunicaciones

esta cámara fue testigo de la comparecencia de la alcaldesa de la junta administrativa de ariñéz donde se ubica

de telecomunicaciones el más potente de álava y nos explicaba

de itelazpi en este caso y la verdad es que su constancia y su dedicación plena

que presentase una demanda que luego tuvo un proceso

hoy podemos decir que esta junta administrativa de ariñez

por la ubicación de este centro y que podemos dar por buena toda la pelea que en aquel momento arantxa hizo y demostró también en esta cámara también luego vino la demanda de la junta administrativa de contrasta donde

una sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco de catorce de julio del dos mil diecisiete desmonta todos los argumentos que itelazpe había utilizado para no hacer efectivo el canon correspondiente por uso de monte público y daba la razón a la diputación foral de álava y a la junta administrativa

en esta cámara se aprobó por unanimidad la siguiente proposición no de ley que básicamente venía a decir que instábamos al gobierno vasco a que activase tanto con las juntas administrativas entidades locales la diputación foral de álava y en la empresa pública itelazpi

activase o que respetando las competencias de cada uno se regulara el uso de los espacios ocupados también insistíamos en que itelazpi tenía que comunicar a las juntas administrativas

cuál era el uso que estaba haciendo qué usuarios de ese espacio tenía itelazpi allí ubicados y que de alguna manera entablase una relación de cercanía hacia estas juntas la verdad es que pasaba el tiempo y salvo la junta administrativa de ariñez y contrasta que ya habían regularizado una con sentencia y la otra también por la tramitación

el resto de juntas no se había movido para nada a la tramitación

de diciembre presentábamos una pregunta en esta cámara donde le decíamos al gobierno vasco que nos contase cuál era la situación y en diciembre de dos mil dieciocho

lo que le estaba contando que existía un ayuntamiento el de aspárrena que percibía desde dos mil seis un canon de cuatro mil doscientos veintiuno euros

que luego dos ayuntamientos y ribera alta habían percibido una compensación

en los años noventa y uno y ochenta y tres y luego lo que les decía el concejo de contrasta y el concejo de

por lo tanto estábamos interpretando y es bastante evidente que el acuerdo que se aprobó en esta cámara

y que nosotros entendíamos que había que impulsar y activar los mecanismos necesarios para que se retomase aquel acuerdo y llegásemos a que vean compensada esa utilización de monte público y tengan unos recursos por la gestión de ese espacio que ellas son las responsables como les decía llegado el año dos mil diecinueve y pasado el tiempo dos años

ámbito lo que nosotros procedía es presentar esta iniciativa para que se regularizase el resto de juntas administrativas que tienen

de centro de telecomunicaciones por parte de itelazpi que se valore cuál es la ocupación y que se pague un canon porque entendemos que es lo justo y lo necesario

del dos mil diecisiete y un después que ahora están en otra disposición que han estado en contacto

con la diputación foral de álava que han estado dos mil dieciocho haciendo ese planning que diputación foral de álava va a asumir

la orden para que sea itelazpi luego quien abone lo que en esa orden se ha fijado con los parámetros que ya tienen establecidos

en junio de dos mil diecinueve y diputación va bastante más lento de lo que correspondía lo que hemos hecho es

de la iniciativa que habíamos presentado se ha llegado a un acuerdo

y que me parece que está valorado tanto con los grupos que estamos en esta cámara como nuestros respectivos grupos en las juntas generales de álava que también tienen algo importante que decir puesto que son los directamente afectados de la gestión que está haciendo la diputación

hemos llegado a un acuerdo que les voy a leer en el que décimos que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a la sociedad pública itelazpi a que junto con la diputación foral de álava

de regularización del uso de los centros de telecomunicaciones gestionados por itelazpi

con el fin de fijar las contraprestaciones correspondientes mediante la oportuna orden foral instamos a la diputación foral de álava

de los centros a las entidades locales alavesas que actualmente no tienen regularizado el uso de los centros de telecomunicaciones

con el fin de fijar las contraprestaciones correspondientes mediante la oportuna orden foral en el punto tercero instamos a la diputación foral de álava

los procedimientos administrativos de los centros de telecomunicaciones ubicados en montes de utilidad pública de álava

y por último lo que hacemos es que este acuerdo se comunique esta proposición no de ley y esta

que tienen centros de telecomunicaciones gestionados por itelazpi lo que hemos conseguido es un compromiso de la diputación foral de álava para que dentro de un año estas entidades que tienen pendiente de regularizar sus centros de telecomunicaciones puedan pedir bueno porque tiene que ser a inicio de ellos de parte

creemos que así nos han valorado también los grupos como decía de juntas

la paciencia que ha tenido a los muchos documentos que le he ido mandando hasta que hemos llegado a este texto

en conseguir este texto nada más muchas gracias eskerrik asko

y voy a hablar voy a empezar hablando un poco de los concejos que como la señora lópez de ocáriz acaba de hablar pero bueno creo que tenemos que

su papel su papel súper importante en el territorio son administraciones locales muy pequeñas de hecho son las más pequeñas son las más cercanas a las personas efectivamente

y de la forma más democrática que se puede son administraciones donde su propio gobierno está ahí de forma voluntaria y donde y su propio gobierno

las administraciones locales que desde luego mantienen el equilibrio territorial garantizan los servicios

son quienes definitivamente hacen territorio son un ejemplo de gobernanza de esa gobernanza que siempre hablamos de una gobernanza para la comunidad pero una gobernanza de lo comunal algo que a día de hoy bueno pues poco a poco se va perdiendo y que desde luego nos toca defender por todas estas razones

entendemos que deben estar al servicio de estas entidades podríamos hablar incluso de discriminación positiva

los concejos son garantías del ya famosos equilibrio territorial que tantas veces hablamos sí en las juntas generales de álava pero también aquí competencias de los concejos lo acaba de decir la señora lópez de ocáriz pero bueno es la gestión y el aprovechamiento la gestión pública de las cosas de los montes gestión mucho más sostenible que la privada no tenemos más que hacer una comparativa con la gestión de los montes con bizkaia y gipuzkoa

ha garantizado una forma diferente de hacer las cosas un aprovechamiento sostenible

esto nos da beneficios no solamente económicos que suelen ser más bien pocos sí medioambientales y desde luego unos beneficios sociales frente a la gestión privada que es la contraria

y casi vamos a hablar de itelazpi de su actitud de su actitud de su nueva asunción de responsabilidades y

itelazpi lo primero que nos viene y nos pone es difusión responsable y a mí me da qué pensar difusión responsable es todo menos lo que itelazpi ha hecho estos últimos años con los concejos en álava desde la creación de itelazpi ha instalado ha ido instalando poco a poco antenas en montes en montes públicos efectivamente de una forma yo diría que poco limpia y de una forma en la que en la mayoría de los casos con los concejos ha sido sin permiso

y que no se nos olvide que ese territorio que ese terreno es privado es como si a cualquiera de aquí en nuestra casa con nuestro chalecito y nuestro jardín viniese alguien nos pusiera una antena

no lo permitiríamos como parte de la propiedad pues con los concejos nos pasa exactamente lo mismo y es más grave no solamente no han informado

por la que anualmente se cobra más de un millón de euros entonces no solamente

es curioso yo creo que es el ejemplo de cómo no hacer las cosas y menos una empresa pública y hoy voy a dar las gracias

porque un concejo meterse en una pelea jurídica contra el gobierno contra la diputación y sobre todo contra una empresa pública pues

voy a hablar de contrasta concretamente la ganó jurídicamente la ganó a itelazpi

pues está bien cuando itelazpi ha demostrado desprecio ha demostrado ninguneo ha demostrado una superioridad incluso moral y estos días hablaba con el presidente que ha sido de la asociación de los concejos me decía que la relación que teníamos con itelazpi era una relación esperpéntica itelazpi nunca ha creído en los concejos ni en su capacidad de gestión

la relación de itelazpi con las juntas generales de álava pues una vez más de ninguneo una vez más de como yo soy una empresa que pertenezco a gobierno vasco donde voy a dar las explicaciones es en gobierno vasco incluso en el parlamento vasco

porque aquí la administración es administración un concejo es muy pequeñita efectivamente es voluntaria

así que la falta de respeto ha sido verdaderamente

y además es que no ha cumplido ni siquiera los mandatos no solamente que ninguneas sino que no cumples los mandatos

en febrero de este año a las juntas generales de álava el último día cuando acabó la legislatura en álava fue sencilla decía por consiguiente tanto el gobierno vasco como itelazpi solo se someterán

entonces señores y señoras estamos perdiendo el tiempo en álava y en los concejos aquí igual no tanto

yo creo que además está siendo así que itelazpi ya está haciendo todo lo que está en sus manos no lo ha hecho hasta ahora y además ayer nos lo reconoció en voz alta

poco a poco lo que está en sus manos y no vamos a confiar solamente en su buena intención en su actitud proactiva

nadie creo que ni en esta cámara ni siquiera itelazpi quiere volver a escenarios anteriores yo creo que nadie quisiera volver al veintidós de junio del dos mil diecisiete que fue cuando aquí aprobamos la moción en la que por fin obligábamos a itelazpi a tomar medidas es muy feo que una empresa pública

privada y que se aproveche de los comunales pero mucho más feo aún es que no respete a las administraciones por muy pequeñas que sean incluso aunque sea legal a mí me parece muy feo decía hace

no fue fácil pero se sacó adelante y los puntos eran muy sencillos se aprobó que si estaba el gobierno vasco a lograr un acuerdo entre itelazpi diputación y los concejos

un canon algo tan sencillo itelazpi bajo los principios de transparencia y publicidad debía informar a los propietarios se instaba a evitar judicializar el proceso

contraprestación con retroactividad bueno han pasado dos años

no está pasando lo que nos hubiese gustado así que esta mañana hemos escuchado aquí el gobierno hace cosas

sí pero hace cosas porque no tiene más remedio hace cosas ni las suficientes ni a la velocidad que quisiéramos ni siquiera por su propia voluntad pero hace cosas bueno vale pues nos alegramos en febrero de este año en juntas generales de álava viendo que las cosas no van tan rápidas como deberían se vuelve a aprobar otra moción a la que

así que dos años después de inacción tanto por parte de itelazpi como por la diputación foral de álava tengo que reconocerlo

el día de la marmota se le puede llamar porque una vez más volvemos a hablar de itelazpi

de hace dos años entendemos que la actitud proactiva que le vamos a pedir a itelazpi también la tenemos los grupos y en eso estamos y yo creo que lo hemos demostrado y bueno pues

del vicepresidente de itelazpi que decía que el cinco de abril ya él había pasado toda la información

entonces bueno creemos que la diputación tiene que mover ficha y desde luego no vamos a perder oportunidad para perseguir y para vigilarlo vaya así que

tenemos que garantizar los principios de colaboración y cooperación desde todas las partes que tienen competencia en este tema

por parte de itelazpi se tiene que acabar sí o sí porque si no volveremos aquí a debatir más de lo mismo más allá de cumplir sus obligaciones como empresa más allá de regularizar situaciones

pedimos lealtad institucional creo que se llama es tan sencillo como respetar al resto nada más pero respetar no solamente sus competencias sino también sus propiedades que en este caso sus concejos las tienen no yo diría que

que se asuma lo que en el dos mil diecisiete se planteó y lo que hoy va a volver a salir

de intento de negociar y yo creo que ha salido bien y porque además el partido popular y euskal herria bildu tanto aquí como en las juntas generales de álava demostramos una vez más que nos preocupan mucho los concejos

del territorio no voy a ir acabando desde luego el objetivo de itelazpi es garantizar esos servicios lo entendemos y además

ni de cualquier manera eso no lo vamos a permitir bukatzeko

la transacción con la idea de no volver a debatir sobre itelazpi y sobre las competencias de cada uno eskerrik asko eskerrik asko

presidenta señorías yo tengo alguna duda de si

este asunto había que tratarlo aquí pero ya que lo estamos tratando aquí

porque yo creo que el problema estaba en dos mil diecisiete y antes pero en dos mil diecisiete esta cámara por unanimidad decidió que había que

la empresa pública itelazpi y los concejos que había que tener una relación de carácter económico

para que los concejos en esos montes de utilidad pública que están bajo su jurisdicción tuvieran una aportación y pudiesen atender a lo que son las competencias de esos concejos aquí en el dos mil diecisiete planteamos que

procedimientos para empezar a retribuir

con ese canon a los concejos y esto se puso en marcha una vez que esta cámara tomó esta decisión poco a poco

porque parece que esto viene aquí de rebote de un debate de las juntas generales de álava y cuanto mejor hubieran hecho las juntas generales de álava con instar

porque el momento procesal de este asunto es que ya hay concejos que están recibiendo esas

que todavía no lo están haciendo pero por qué no lo están haciendo no cobran porque itelazpi no quiere pagar no cobran porque no hay un procedimiento establecido para resolverlo

porque de las veintitantas órdenes forales que tiene que aprobar la diputación foral de álava para resolver y empezar

esta es la historia entonces yo sobre otro tipo de elementos que se han vertido aquí en relación a cuáles son las relaciones institucionales que tiene itelazpi o su comportamiento con las juntas generales

no le veo en este momento demasiado interés ahora no es

el que va a ejecutar el que va a formalizar las órdenes forales o las hace la diputación foral de álava o seguirán sin resolverse las prestaciones

por eso decía que no se si había que tratar esto hoy aquí

la comparecencia de ayer quedó claro para todo el mundo quedó claro cuál era la voluntad de itelazpi quedó claro que ya estaba hecho el procedimiento

solicitado o había requerido a la propia diputación foral de álava

al acuerdo que emanaba de este parlamento y que fue el que produjo

defender a itelazpi porque creo que su conducta en los años anteriores pues

y que ya lo hicieron ayer en las juntas generales pero en este momento

sino que está en la diputación foral de álava bueno si este parlamento sirve para que

erabilera publikoko mendietan dauden itelazpi ren telekomunikazio zentroei buruzkoa tratamos de nuevo un asunto

en el que alcanzamos un acuerdo por unanimidad gracias al esfuerzo de todas las partes en el que hubo muchas cesiones y sobre todo el objetivo común era

iniciativa de hoy es el mismo que es la regularización de los centros de telecomunicaciones que se hayan en los montes de utilidad públicos de

pero la situación actual no es para nada en ningún caso la situación de hace dos años

se ha conseguido salir de aquel atasco o laberinto se avanza y sobre todo se avanza fuera de los tribunales

entendemos que no con la celeridad que a ninguna de las partes le hubiera gustado ni a itelazpi

porque es verdad que algunas entidades locales parece que prefieren quedarse como están

la celeridad o los plazos se deben a que hay que tramitar unos procedimientos administrativos que tienen sus tiempos y los medios materiales y personales también son los que son

no puedo compartir para nada yo pensaba que hoy teniendo un acuerdo pues es verdad que hay que mirar un poco atrás pero yo pensaba que íbamos a mirar más a futuro y no puedo compartir para nada la visión que continuamente y que hoy

en la que había posturas contrapuestas un asunto en el que había muchos niveles institucionales de euskadi afectados desde la administración general de euskadi con su sociedad pública diputación foral de álava y entidades locales menores con ámbitos competenciales diferentes pero en ningún caso

superioridad ni jurídica ni de actitud

hubo sobre todo hasta junio de dos mil diecisiete posturas

hubo una superioridad o una prepotencia que hoy aquí se ha querido hacer ver y anteriormente además se ha tratado siempre con lealtad y respeto institucional y colaboración y cooperación

pues se quería hacer prevalecer unos intereses particulares a un interés general a un interés de cohesión

pero bueno esa fase esos escoyos se superaron y ahora estamos en otro momento así ese acuerdo de junio de dos mil diecisiete fue un punto

que todos nos comprometimos a avanzar hoy hemos vuelto a alcanzar un acuerdo con el grupo proponente al que posteriormente se ha unido eh bildu y que

previsiblemente lo apoyará también entiendo que no era necesaria

proposición no de ley hoy en el parlamento porque también en lo que ha derivado principalmente se refiere a las juntas generales de álava y entiendo que era un asunto que se podía resolver allí pero aquí lo tenemos y hemos conseguido

haciendo un esfuerzo y con flexibilidad de nuevo por todas las partes en el acuerdo le solicitamos a itelazpi que impulse los procedimientos de la regularización

de itelazpi y quedó claro que su actitud es que el trabajo de itelazpi es proactivo y que actúan con transparencia

total disposición de la diputación foral de araba que es a quien corresponde tramitar los expedientes

se puedan pagar en cuanto los procedimientos estén resueltos

itelazpi está pagando en cuanto esos procedimientos están resueltos no se está recurriendo ninguna orden foral e incluso los cánones se pagan y

por lo tanto lo que corresponde a itelazpi está completo y por otro lado pedimos

que adquiere unos compromisos unos compromisos con unos plazos exigentes pero

que resuelva los procedimientos bueno pues estas dos cosas ya las está haciendo

y además ha mantenido reuniones con las entidades locales que mostraron

tampoco han querido moverse de la situación en la que estaban por diversos motivos y en cuanto a los expedientes se están tramitando bastantes alguno ya se ha resuelto

y los otros algunos están en tramitación con la capacidad que ha entendido con la programación que la diputación foral de araba ha entendido que tenía capacidad tampoco puedo compartir

que se hable de una ilegalidad o que se haga ver que las

esas torres existen están en el territorio desde los años sesenta que es verdad que han tenido modificaciones en ellas pero

esas torres existen antes de que existiera la propia itelazpi en la mayoría de las ocasiones entiendo que los concejos o el territorio lo aceptó en el ochenta y cinco se traspasó

al gobierno vasco y no creo que las diputaciones forales y en este caso la diputación foral de araba pudiera traspasar al gobierno vasco algo ilegal otra cosa es que en este momento

se estime conveniente una regularización una regularización en un sentido de ordenar y de actualizar lo que existe

alberga funciones necesarias como emergencias seguridad protección civil meteorología

o internet y hace llegar a todos los hogares estos servicios hasta al más aislado así fomentando la cohesión la famosa cohesión

y equilibrio territorial si una sociedad de este tipo no prestara esos servicios habría hogares que no tendrían estos servicios por lo tanto no hay aquí un negocio hay una labor social clara y por otro lado se habla de que

esas instalaciones albergan operadores privados por supuesto albergan a operadores privados nunca se ha ocultado

la ley general de telecomunicaciones y por otro lado también porque se estima que por

medioambiental para que no proliferen torres y optimizar las instalaciones ya existentes y en cuanto a los ingresos

que esas instalaciones tienen ingresos tienen ingresos públicos y privados que por cierto se publican y que también se han dado a algún grupo parlamentario de esta itelazpi los ha facilitado algún grupo parlamentario de esta cámara pero los ingresos no quiere decir que todo sea beneficio también tienen costes en cualquier caso en los caso que hay beneficio porque no todos los la mayoría de las instalaciones de araba casi podríamos decir que son deficitarias

beneficio desde luego se reinvierte o se revierte en una labor social por lo tanto no es correcto esa

de negocio de negocio de itelazpi de un afán economicista

por lo tanto bueno pues poner en valor esta valor pública

con el deseo de que este expediente puedan culminar porque todas las partes están interesadas y nosotros también eskerrik asko eskerrik asko larrauri

en esta cámara un debate interesante sobre la despoblación del mundo rural en el cual más o menos todos los grupos llegamos a un cierto acuerdo a un cierto consenso

en la prestación de una serie de servicios que son servicios para toda la sociedad bien sea el mantenimiento de caminos

a disposición de las otras administraciones de un suelo en este caso de un suelo de un monte

ubicar en él una serie de infraestructuras en ese debate la semana pasada como digo teníamos un cierto consenso de que esa prestación de servicios

y claro cuando nos encontramos con un problema concreto con un ejemplo concreto entonces ya el pasar de la reflexión teórica a la práctica es más

para posiblemente para algunos grupos el debate que ha traído la señora lópez de ocáriz y yo le agradezco no creo que venga por la cuestión de la autorización porque habiendo una norma foral de montes que deja claro que estas instalaciones estos repetidores tienen que tener autorización

el objeto del debate yo creo que tampoco es sobre la contraprestación económica que tiene que aportar itelazpi por aquí en álava sus treinta y tres instalaciones

no tiene que ser ese el debate porque esa cantidad estará basada en condicionamientos técnicos que lógicamente les corresponde a las administraciones y a los técnicos competentes

este debate aquí es realmente la actitud de itelazpi la actitud que

yo califiqué de soberbia institucional derivada de la respuesta que le da

para evaluar su trabajo y que el único ente que puede evaluar su trabajo que puede fiscalizar su trabajo es el parlamento y obviamente eso es lo que hace que

de botella administrativo ahora mismo no está en itelazpi ya está en la diputación foral de álava

pero como digo lo que tenemos que evaluar es la actitud podemos evaluar la actitud presente que ayer se nos dijo que en un alarde de generosidad

y eso ya da una buena medida de cuál es el cambio de actitud que ha tenido tampoco vamos a prejuzgar cuál será la actitud futura y a mí sí me gustaría que esta

sirviera para de una vez por todas alinear a itelazpi con el resto de instituciones del país para dar un servicio administrativo digamos

el resto de instituciones pero sí es importante hacer resaltar hacer ver por qué hemos llegado hasta aquí porque la señora larrauri dice que

y tenemos que recordar que itelazpi mantuvo un pulso jurídico hasta el final alegando primero que no era necesario la autorización porque era un servicio público osa que no es desde año dos mil tres

no existía un beneficio económico cosa que tampoco es verdad porque itelazpi recauda más de doce millónes de euros al año por la prestación de los servicios y el canon el canon que tiene que pagar a los concejos a las juntas administrativas apenas supera los cien mil euros con lo cual estamos hablando de un uno por ciento

no ha querido pagar en ningún momento y tal ha sido su actitud proactiva que

de los peritos de los expertos de la universidad del país vasco

si efectivamente allí había un beneficio económico una utilidad económica o no tardaron dos años siete meses y trece días en permitirles el acceso

y en ese sentido no nos vamos a pronunciar pero evidentemente eso es lo que trae este debate aquí

en su página web el código de buen gobierno y código ético dice que itelazpi procurará el desarrollo económico social y cultural de la sociedad vasca

habla de la sociedad vasca y dice que es una empresa eficiente referente y que aporta valor a la sociedad

si lo que busca es el desarrollo de nuestra sociedad de nuestras comunidades rurales no se hable más paguen y listo muchas gracias eskerrik asko

sí brevemente en primer lugar señor becerra para agradecerle el apoyo

si esta iniciativa llega a esta cámara es porque hay un punto

ha cumplido ese punto lo retoma la iniciativa de juntas en enero lo aprueban

ejerza lo que le manda el punto y él dice que no a las juntas

sencillamente traemos la iniciativa a esta cámara para que efectivamente lo explique

tener esa relación con itelazpi como empresa pública vasca creo que no podemos ser más humildes sencillos

despectivos estamos siendo tratar de resolver una cuestión que se ha planteado y que parecer ser que esta es la cámara donde itelazpi también quiero decir

que cada uno requería si en la interpelación que se le hace al diputado de álava en juntas en febrero cuenta la programación que está teniendo con itelazpi y cómo va a ser él el responsable de comunicar e informar a las juntas

probablemente no porque ya está establecido un mecanismo pero no se cuenta entonces tampoco cuenta

por intervenciones entonces si ejercieran la transparencia en cada momento probablemente muchas de las cosas

pero esto es consecuencia de un no cumplimiento del acuerdo de veintidós

que se vuelve a acordar en juntas generales de álava que no es atendido por itelazpi y que lo traemos aquí porque itelazpi dice que solo atiende aquello que se apruebe aquí

creo que es meridianamente claro y transparente por qué traemos la iniciativa aquí

no estaríamos aquí claro por eso estamos muchas gracias a todos

nada brevemente agradecer el tono a pesar de que no compartimos que haya tenido que llegar hasta aquí esta iniciativa agradecer el tono de la señora

y al señor becerra decirle que entiendo que él no participó en el debate del veintidós de junio de dos mil diecisiete y bueno nos ha tenido que hacer

que todas formas las verdades o la historia hay que contarla completa y

a quién es imputable porque efectivamente no es imputable

y por otro lado hay mucho empeño en el tema de los ingresos y posibles beneficios que no siempre los hay

desde luego sí estamos intentando relacionarlo con lo que hay que pagar a las juntas administrativas es que los cánones no se calculan en función de los ingresos se calculan

acuerdo a las sentencias a las sentencias de julio de dos mil diecisiete los cánones no se calculan en función de los ingresos sino a otros parámetros objetivos principalmente relacionados con la ocupación

el gobierno ejecutivo de yaundé en su objetivo de subyugar

en una política de tierra quemada que ha causado numerosas víctimas inocentes por otro lado grupos violentos de esa región amparándose en las protestas han causado graves crímenes con centenares de víctimas de la población

centro para los derechos humanos y la democracia en áfrica ha contabilizado hasta marzo

pueblos quemados y calcinados causando centenares de muertos y miles de desplazados

en nigeria necesitadas de urgente ayuda humanitaria ante esta grave situación de violación

uno denuncia y reprueba esta constante vulneración de los derechos más fundamentales mediante el ejercicio de una violencia cruel y desproporcionada contra la

población civil que ha provocado una grave crisis humanitaria pero también los secuestros pasados de estudiantes y profesores o el asesinato de funcionarios y policías dos expresa su reconocimiento solidaridad y apoyo a las víctimas y a los allegados de estas masacres